la teleasistencia domiciliaria es un servicio que permite la permanencia de las personas usuarias en su medio habitual de vida evitando su desarraigo nuestros y nuestras mayores

en su lugar habitual de residencia el potente servicio de teleasistencia existente les permite permanecer en sus hogares en unas condiciones seguras el máximo tiempo posible es un servicio altamente valorado tanto por las personas usuarias como por sus familiares y profesionales que lo atienden

conjuga la voluntad de las personas mayores de permanecer en sus hogares en unas buenas condiciones y el máximo tiempo posible con la tranquilidad de sus familiares y la sociedad en general que sabemos que en el caso de ocurrir un imprevistas serán

altamente cualificados teniendo la certeza de que se pondrán en marcha los recursos necesarios para atenderles segurtasunerako edo osasunerako

momentuan profesional ezberdinengatik beharrezko arreta hartzen dutelarik por lo tanto

y como hemos conocido que el mismo se expandirá tanto en número de personas usuarias como en servicios ofrecidos

la teleasistencia domiciliaria es un servicio público destinado a personas mayores o discapacitadas

mediante la atención inmediata de profesionales especializados que puedan aportarles consejos para recuperar el control de su situación

la ayuda necesaria la colaboración con el departamento de salud ha sido determinante en el buen desarrollo de esta iniciativa de tipo socisanitario que se encuentra en continuo crecimiento no solo se da un crecimiento de personas usuarias

los avances tecnológicos están permitiendo mejorar el acompañamiento que se realiza al otro lado del botón del medallón o de la línea

y así nos hemos marcado retos para estos próximos años el colectivo de personas mayores es sin duda el objetivo principal de la prestación del servicio además la ampliación de la cobertura a personas con discapacidad y con enfermedad mental

el desarrollo de un modelo de atención personalizado para la actuación preventiva en soledad caídas seguridad y apoyo al entorno socio familiar es otra de nuestras líneas de trabajo

es necesaria la continuidad de la cooperación sociosanitaria desde un modelo centrado en la persona y mediante la coordinación efectiva

siempre priorizando la coordinación con los servicios sociales de atención primaria pero el mayor reto que tenemos por delante es el de prever las necesidades de cada persona y buscar la mejor respuesta siendo eficientes y lo vamos a hacer valiéndonos de las nuevas tecnologías

se plantea desde una mirada al futuro se va a digitalizar el sistema antes analógico lo que permitirá dotar de nuevas herramientas a las personas

la digitalización aplicada a la teleasistencia posibilita soluciones siempre conectadas más rápidas adaptables y capaces de manejar gran cantidad de información además de incorporar

de forma progresiva como ha sucedido en otros países como son suecia o australia no depende solo de nuestra voluntad

en el segundo semestre del dos mil diecisiete el servicio público de teleasistencia de euskadi llevará a cabo un primer despliegue

a través de las redes móviles de última generación y en la medida de nuestras posibilidades

el colectivo de profesionales del servicio de teleasistencia se ha trasladado también a una nueva sede donde cuenta con herramientas que servirán para avanzar en el enfoque sociosanitario el servicio de teleasistencia es fundamental para que más de cuarenta y tres mil personas puedan seguir viviendo de manera autónoma e independiente en sus viviendas no solamente

es un soporte fundamental para las familias y las personas cuidadoras

y el índice de satisfacción de los usuarios de los cinco puntos de máximo de la nota

cuatro coma cuarenta y uno puntos el servicio de teleasistencia constituye

y en el que euskadi ofrece muchas muestras de iniciativas y de compromiso mila esker

yo para tener una relación bilateral en pie de igualdad tengo que ser estado eta hori titular batera eramanda tenemos que ser estado para que la bilateralidad con españa

con un calendario de trabajo aprobado esta misma semana y planteo respetar este foro específico

y avanzar con un espíritu constructivo para alcanzar un acuerdo interno profundo amplio y plural esta es nuestra misión y responsabilidad en este tiempo

disponemos de herramientas políticas económicas e institucionales

lehendakari jauna mahai buru andrea legebiltzarkideok sailburuak el anteproyecto de presupuestos que tanto ha gustado al partido popular en su disposición sexta y séptima introduce dos recortes en la cuantía de la renta de garantía de ingresos en particular la séptima se basa en una disposición del gobierno de rajoy

en el derecho a la garantía de ingresos al salario mínimo interprofesional podría explicar usted por qué quienes dicen poner pie en pared contra las intromisiones del gobierno central se valen precisamente de una recomendación de ese mismo gobierno para desvincular la rgi del salario mínimo
recortándola y precarizando las vidas de más de sesenta y tres mil familias eskerrik asko

antes que los acuerdos que se hayan adoptado en otros foros y en este sentido la decisión que ha adoptado el gobierno vasco ha sido incrementar el presupuesto para la renta de garantía de ingresos precisamente tal y como se contempla en el proyecto de presupuestos y en cuanto al acuerdo del quince de diciembre

este parlamento ha instado al gobierno a promover un pacto social de amplio consenso para consolidar la financiación y para garantizar la sostenibilidad del sistema vasco de protección social

de garantía de ingresos el departamento de empleo y políticas sociales presentará el informe antes del día quince de mayo tal y como se ha solicitado por este propio parlamento el gobierno va a cumplir este compromiso y entre tanto los presupuestos insisto contemplan ya un incremento un incremento de las partidas dirigidas

en particular esta se incrementa para mantener el poder de las personas perceptoras usted lo decía ayer en el debate que se sustanciaba ayer el compromiso social de este país durante treinta años

dedicamos más de quinientos millónes cada año a atender a las personas que carecen de ingresos esto supone el cuarenta por ciento de lo que se invierte en todo el estado el riesgo de pobreza por ejemplo según los datos del eustat que estos días se han publicado en euskadi es similar al de alemania

como se hace la solidaridad de la sociedad vasca y digo de la sociedad vasca en su conjunto no solamente de las instituciones sino también de la sociedad en general

este país es solidario con quien más lo necesita y así lo entiende su partido también que aspira a instaurar en españa un programa que es curiosamente menos ambicioso que el que aquí tenemos el planteamiento que usted

yo creo que carece de realismo que no es sostenible y entre tanto el gobierno va a seguir defendiendo que el empleo es la mejor política social se trata de estimular la

y favoreciendo la incorporación al mercado laboral eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna guanche

en cuestión ni el sistema ni la sostenibilidad del mismo eso ya en su día lo hicieron sus socios del pse y hoy lo hacen cada día sus nuevos socios del partido popular los del pse cuando

nosotras desde luego creemos en el sistema y creemos que podemos contribuir a su mejora y que su elección sobre la rgi así como la elección que hace de compañeros de viaje

a quienes menos capacidad tienen para defenderse en todo caso creemos que la sostenibilidad del sistema no debería hacerse a costa de las personas que peor lo están pasando

que necesitan esta prestación social y ella decía literalmente

si ustedes pueden encontrar veinticinco millónes para dejar contento al partido popular cómo no lo van a conseguir para mejorar las condiciones de vida de gran parte de la ciudadanía una vez más

por ejemplo podrían empezar a sumar una parte de este dinero recortando en asesores y altos cargos así el esfuerzo y el ejemplo empezaría por el gobierno

quienes pudiendo no aplicar este recorte han elegido hacerlo nadie les obligaba es una decisión política y es una cuestión de voluntad y además se ha hecho sin esperar al acuerdo adoptado en este parlamento a partir como usted decía del quince de mayo se pongan usted como se pongan esto es un recorte y si tienen duda les emplazo a releer el decreto setecientos cuarenta y seis barra dos mil dieciséis donde dice claramente

disposición expresa en contrario de las propias comunidades autónomas márgenes tendrían pero no lo quieren aplicar su decisión tendrá afectadas directas más de quince mil personas con pensiones mínimas más de doce mil con empleos precarios esos de los que ustedes tienen la cara dura de decir

lo que desincentiva el empleo señor lehendakari es que encontrar un trabajo de quince días

lo que desincentiva el acceso al empleo es que el empleo no cumpla con unos mínimos de dignidad y de calidad y esa debería ser su prioridad

pregunte a sus consejeros y consejeras si con un quince por ciento menos de salario dejarían su trabajo les aseguro que no lo harían y ni con esas llegarían ustedes a imaginar

mire espacios de mejora sí demagogia no señora guanche

en euskadi gran parte de los perceptores de la rgi ya cobran más que el salario mínimo interprofesional

está por debajo de la media en europa sabe que si se aplica el incremento del quince por ciento que usted propone todos los perceptores cobrarían más que el salario mínimo

sabe que con su propuesta señora guanche una persona podría cobrar más sin trabajar que trabajando sí señora guanche realismo demagogia no

acordamos con ustedes también ustedes se consideran socios del partido nacionalista vasco cuando acordamos con ustedes en las iniciativas parlamentarias

y de eso se trata con el compromiso de presentar el informe sobre la renta de garantía de ingresos que es el compromiso en este parlamento ahora bien reconozca lo que esta sociedad ha hecho en treinta años y sobre todo contribuya a primar medidas que generen empleo que es la mejor política social eskerrik asko

señor lehendakari consejeras y consejeros señorías buenos días a todos y a todas señora consejera de trabajo y justicia es notorio porque así lo ha expresado usted en varias ocasiones la primera cuando expuso ante la comisión correspondiente las líneas generales de actuación de su departamento para esta legislatura y nuevamente

que una de las prioridades de su labor va a ser la lucha contra el fraude laboral soy consciente de que la crisis económica las nefastas políticas puestas en marcha por la derecha para afrontarla han provocado desigualdad en muchos terrenos incluido el laboral y precisamente se ha cebado especialmente con las mujeres

ha hecho que nos encontremos con recortes en derechos y condiciones de trabajo una de las expresiones más alarmantes de estos recortes

la modalidad de contratos a tiempo parcial que también quiero recordar somos las mujeres las que firmamos la inmensa mayoría de estos contratos

todos y todas somos conscientes de que este tipo de contrato es susceptible de manipulación

y se haga cumplir al trabajador o a la trabajadora otra cosa muy diferente estamos por tanto ante una posibilidad real de que se cometa fraude laboral en línea con lo que usted ha expresado reiteradamente hace unos días anunció que había dado instrucciones a la inspección de trabajo dependiente de usted para que ponga marcha una campaña para la revisión de los contratos a tiempo parcial que se han formalizado en nuestra comunidad autónoma

saludamos con agrado esta medida y la animamos a que continúe en la labor emprendida para atajar el fraude laboral

que además de reivindicar más autogobierno hay que saberlo usar exprimiendo cada competencia como es el caso después de haber asumido la transferencia de la inspección de trabajo es una medida que seguro revertirá en mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras

con situaciones irregulares en el ámbito laboral no obstante tengo el convencimiento

en que en este sentido queda mucho camino por recorrer que se necesita la implicación y la colaboración entre la administración y los agentes sociales para solucionar el problema que es imprescindible que la sociedad en su conjunto tome conciencia

el fraude laboral y facilite acabar con él usted ha anunciado una iniciativa quiero que nos explique a todos y a todas su alcance le ha puesto a la campaña un límite temporal dos años

que está inmersa en un proyecto global por eso le pregunto a la vista de la campaña de revisión de contratos a tiempo parcial

tiene previsto su departamento realizar otras campañas de la inspección de trabajo específicas para determinados colectivos de trabajadores que sufren especialmente el fraude laboral

como usted bien ha dicho la lucha contra el fraude laboral es uno de los objetivos prioritarios que nos hemos marcado en el gobierno vasco y por ende en el departamento de trabajo y justicia para esta legislatura cuando alguna persona física o empresa pretenden mediante el engaño económico a la administración obtener un beneficio particular lo que estamos provocando

cuando alguien hace un contrato a tiempo parcial pero en realidad lo que está modificando para que se trabajen más horas de las previstas en el contrato lo que está produciendo es un perjuicio directo

nuestras haciendas vascas no podrán recaudar lo que es justo y la tesorería general de la seguridad social no podrá ingresar lo que le corresponde en suma se está causando un quebranto a toda la sociedad

el departamento de trabajo y justicia hemos decidido emprender una campaña para minimizar en la medida de lo posible este fraude lo primero que quiero decirle

de la situación por nuestra parte y en el contraste con las cuatro organizaciones sindicales más importantes de nuestro país y con la organización empresarial más representativa señora sánchez en el departamento de trabajo y justicia somos conscientes del incremento que en determinados sectores productivos como en comercio y hostelería está teniendo la modalidad de contrato a tiempo parcial

en euskadi se han formalizado en el mes de enero sesenta y ocho mil doce contratos temporales de los cuales veintiséis mil trescientos catorce lo han sido a tiempo parcial

el sesenta y seis por ciento han sido para contratar a mujeres en conclusión pensamos que hay personas y sectores más vulnerables a este tipo de fraude

de inspección para revisar este tipo de contratos contrastar los mismos con el ejercicio de la actividad

ilícitas pero puedo asegurarle señora sánchez que esta es solo una de las actividades que van a desarrollar los cuarenta y cuatro inspectores y catorce subinspectores que dependen del departamento que dirijo por otra parte quiero resaltar que estos profesionales se coordinan perfectamente con los no transferidos dependientes del estado con lo que se hace más eficiente la labor inspectora

van a constituir un eje fundamental de trabajo para toda la legislatura conocen ustedes nuestra decisión de implantar a través de la web un buzón contra el fraude laboral para aquellas personas trabajadoras de sectores con baja

o donde la presión de los empleados es elevada para que puedan denunciar situaciones irregulares nuestro compromiso es difundir este buzón e investigar todas las denuncias también vamos a poner énfasis en analizar las modalidades de subcontratación los extremos de la intermediación laboral

para la integración laboral de personas con diversidad funcional el examen de las condiciones de trabajo detectar posibles incumplimientos en materia salarial discriminaciones a personas inmigrantes

serán otras de nuestras prioridades impulsar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el mundo laboral combatiendo la discriminación o las condiciones laborales así como el acoso laboral y por razón de sexo aspiramos a una sociedad vasca con más empleo

para que sirva para dignificar la vida de todos y todas los que acceden a él eskerrik asko eskerrik asko san josé andrea

gracias señora presidenta señor lehendakari consejeros señor consejero buenos días los vascos hemos realizado una renovada apuesta por potenciar nuestro sector turístico

el comercio la permanente mejora de los servicios las últimas estadísticas publicadas por el instituto nacional de estadística evidencian que el país vasco

extranjeros por el contrario ocupa el penúltimo puesto como destino turístico elegido por los turistas

estos datos evidencian amplios espacios de mejora y oportunidades para que el sector turístico gane atractivo en el país vasco

desde el grupo popular entendemos que se deben de aprovechar las ventajas que también en el sector turístico nos ofrece la marca españa referencia líder en el mundo

comportamiento deficitario del turismo de residentes en españa respecto del destino euskadi para preguntarme sobre la colaboración con la marca españa permítame primero que le haga una precisión

que maneja de la encuesta de turismo de residentes del tercer trimestre

a euskadi en una posición baja no es exactamente la penúltima pero bueno una posición baja efectivamente

el atractivo turístico de un destino por ejemplo en este caso

no son buenos por tres razones primero porque esa encuesta mide viajes no mide turistas segundo porque esa encuesta incluye a los residentes dentro de la comunidad autónoma y tercero porque incluye también

con lo cual una comunidad autónoma grande en extensión y en población acaba pareciendo alta solamente por el movimiento interno

de hecho la mayor parte de los movimientos de viajes que se computan en esa encuesta se refieren a movimientos internos de residentes dentro de cada una de las comunidades autónomas por eso no es raro que una comunidad pequeña como euskadi aparezcan en un nivel

es mucho mejor la encuesta de ocupación hotelera también del instituto nacional de estadística

y si observamos esos datos referidos a los residentes en españa el total

suponen un tres coma cinco por ciento del total lo cual nos deja en la décima posición tenemos por detrás comunidades turísticas como asturias o baleares

todo esto no significa que efectivamente tengamos espacios de mejora

porque se refiere al mercado interno o al mercado externo espacios de mejora efectivamente tenemos la colaboración por ejemplo en la proyección exterior

pero el criterio y el objetivo del departamento como además expresé en comparecencia parlamentaria es fortalecer y

porque el objetivo fundamental es el de conseguir atraer turistas hacia

señor consejero me ha dejado preocupada no le parece una oportunidad la marca españa bueno pues para el partido popular sí nos

importante y necesario vincular la marca euskadi con la marca españa debemos subir de estereotipos que resten que no aporten la apuesta por las marcas euskadi y

sino que es necesaria para que el sector turístico de euskadi pueda beneficiarse de las fortalezas que aporta

la marca españa ocupa en la eficacia de la estrategia en el sector turístico de igual manera aporta en el sentido interno dentro de la promoción interna como en el plano internacional la marca españa

de estados unidos por lo que entendemos desde el grupo popular que colaborar activamente con la marca españa puede ayudarnos a conseguir que el turismo en euskadi

económica no es bueno que hagamos algunas cosas que hacemos como es

separados euskadi y españa cada uno por su lado por qué no

la colaboración con la marca españa y la coordinación con las administraciones competentes de la comunidad autónoma vasca nos puede permitir dar mayor visibilidad a todos nuestros destinos turísticos nuestras fiestas eventos congresos

ofertas de productos turísticos el turismo cultural de reuniones el de naturaleza el de cruceros

turismo rural turismo de playa gozamos de los más diversos y diferenciados recursos turísticos y sin embargo no ocupamos buenos espacios

estamos por debajo las encuestas sabemos todos que

no ocupamos buena posición sin embargo tenemos recursos fantásticos por lo tanto señor consejero debemos apostar por la colaboración euskadi españa porque nos posiciona en unos ámbitos que solos no llegamos a conseguir y nosotros tenemos que conseguir que el sector turístico sea un sector de la industria económica de este país potente porque tenemos recursos porque nuestro sector está haciendo un esfuerzo y porque tenemos que darle la mayor oportunidad tenemos que colaborar ahí nos va a encontrar al partido popular a trabajar porque el posicionamiento del turismo en el país vasco esté en todos los rincones del mundo todo el mundo viaja todo el mundo quiere viajar todo el mundo es potencial cliente

señora lópez de ocariz insisto diferencia entre colaborar con la marca españa y colaborar con la infraestructura de promoción turística exterior

en turismo como es españa de hecho en fitur

una reunión con los responsables de las oficinas exteriores de turismo de españa para fortalecer la promoción

en el exterior la colaboración con esa infraestructura de promoción nos ha dado ya la organización de tres press trip y de dos fam trip con

en distintos países y en cuanto a la presencia en ferias este año llevamos ya en

en enero lo hemos hecho con turespaña igual que el año pasado

este mes y estos días de ayer al domingo lo estamos haciendo en paris

hemos hecho una pregunta pero quiero dejar antes de empezar que no es una pregunta para buscar defectos para que sea agresiva para nada de eso y por qué no porque vamos a ver estamos en un momento

pero a mí me suele venir a la cabeza el dicho popular que dice que el diálogo siendo algo absolutamente positivo también puede ser un diálogo de sordos

de este ámbito hasta un diálogo de besugos entonces nosotros lo que nos queremos es que en este ámbito

que en realidad lo único que busca es descalificar al adversario

las cosas que lógicamente no se puedan hacer bien etcétera etcétera nosotros creemos en el diálogo de buena voluntad y ese es el diálogo que queremos ofrecer

además lo dije ayer la política se hace de hoy para mañana

etcétera y nosotros en eso estamos vamos hoy a enfrentarnos a los problemas y vamos a tirar para adelante y desde luego para eso hay que hacerlo juntos

no es por buscar las cosquillas o buscar un ámbito en el que este gobierno esperemos que coyunturalmente no ha tenido los mejores resultados no lo hacemos porque la educación primero

es vital yo le dije a la señora consejera que probablemente estaba en el ámbito más difícil de gobierno porque trataba con personas

hay que hacer las cosas bien pero se trata con piedras aquí no aquí tratamos con personas y tratamos con el futuro y nosotros estamos preocupados por esos aspectos de la educación y tenemos que incidir en ello pero sobre todo porque aunque todos quisiéramos que la educación fuera un punto de encuentro en estos momentos

es un campo de confrontación en él se están confrontando

como sociedad y pulsiones que en nuestra opinión nos retrasan nos dificultan el avance la primera pulsión es una en la que les vamos a poder ayudar pocos

centrífuga que para nosotros es una pulsión hacia el aislamiento

y en ese sentido hacia pobreza social y empobrecimiento de capital social que es un concepto que usted nombró es un concepto que a mí también creo que es vital el que seamos capaz de unirnos y tener propósitos comunes

en la que no les vamos a poder ayudar mucho porque conocen nuestra forma de pensar pero luego tenemos otra pulsión que también es una amenaza que es la pulsión al cambio de sistema

esta pulsión desde luego reconociendo que el sistema en épocas de crisis ha sido muy deficitario o sea no hemos respondido bien y que por tanto el sistema hay que reformarlo pero da margen a aquello que hemos llamado y no quiero

antisistema el otro día tuvimos la oportunidad en la comisión de recibir a los sindicatos yo

antisistema les pedí que me pusieran un ejemplo donde con un sistema diferente los ciudadanos hubieran alcanzado un mejor nivel de bienestar

se levantó una mano entre los sindicatos y dijo pues la unesco ha dicho que cuba es el que más ha progresado en no sé qué

chance para contestar pero pregunté y queremos vivir como en cuba yo creo que no este sistema con todos sus defectos con todos sus fallos es el que proporciona un mejor grado de libertad y de bienestar o de oportunidades y

bueno lo primero es decirle que en el campo de la educación queremos saber sus planes porque queremos estar en ese pacto

que ustedes proponen porque queremos que

no estamos satisfechos con este modelo pero cogemos una palabra de la consejera que dice estamos ante un nuevo paradigma

estamos ante un nuevo paradigma y entonces en este pacto por la educación queremos estar y queremos estar para defender unos valores básicos que esa pulsión que tenemos hacia el antisistema

amenazan el modelo vasco y creo que ahí nos podemos encontrar con ustedes

muy sencillo en todas las comisiones que estoy si hay algo

hacia la educación concertada y claro es que no entendemos por qué se le tiene esa manía a un tipo de educación que eligen la mitad de los ciudadanos nos parece una agresión

y una cuña contra un sistema que permite las libertades de elección y que permite el desarrollo y claro aquí parece que hay que justificarse como cuando se habla del euskera no no por favor que yo soy euskaldun que mis hijos son euskaldunes hay que pedir perdón pero no quiero sí voy a decir que nuestro portavoz se ha educado en la escuela pública vasca

esto se va a tomar como un ataque a la escuela pública vasca pero no

que es la protección de una educación financiada públicamente en el que los padres tienen la posibilidad de elegir lo que le quiero decir con todo esto es que más que una pregunta

en las explicaciones de la consejera y entiendo que vaya usted por ahí lo que quiero decir es que en estos momentos

es un campo no quiero decir de batalla pero sí de confrontación es uno de los campos

que detienen nuestro capital social más vivas están y nosotros porque mire podíamos decir bueno pues sus compañeros de gobierno

en las comisiones y vamos es que son iguales

el otro día le tuve que decir al señor pastor que no está aquí que vale él estaría todo por la escuela pública que se quitará los conciertos

están agradecidísimos a la defensa que hago yo de la concertación porque la mayoría de sus compañeros llevan a sus hijos a la concertada pero lo que quiero decir sí sí que es verdad se lo dije y es cierto y si quiere le doy la relación de nombres por lo menos de guipuzcoanos

entonces lo que quiero decir es que esta pregunta entiéndala para establecer un diálogo de buena voluntad

que lo único que llevan es a desgastar al contrario

el intento común avance luego en la siguiente intervención podré decirle concretamente qué cosas nos preocupan más qué cosas nos preocupan más pero desde luego si tenemos que conseguir un mínimo de capital social y si tenemos que conseguir un mínimo de tirar para adelante

por unas pulsiones que nos frenan en una de ellas no le vamos a poder ayudar pero desde luego en la otra sí y tiene usted nuestra oferta

estoy un poco sorprendida señora bengoechea porque cogiendo la pregunta

toda su disertación me ha cogido bastante descolocada

tal y como trasladé en mi reciente comparecencia ante la comisión de educación para la presentación de las líneas estratégicas de mi departamento para la presenta legislatura y más recientemente en esta cámara

dicha actuación se marca dentro de la estrategia de euskadi dos mil veinte para el desarrollo humano sostenible que fue presentada con todo detalle por el lehendakari

para la presente legislatura y que en el marco de sus ejes estratégicos no solo busca la mejora de nuestro sistema educativo sino su excelencia una educación de excelencia para garantizar un equilibrio social

con este objetivo nos proponemos impulsar un modelo de educación integral adecuada a la ciudadanía vasca del siglo veintiuno en la que se convine la cultura científica y las humanidades que se complete con un aprendizaje a lo largo de la vida y en el que se dote al alumnado de una visión crítica y trasformadora de la realidad

consensuada integradora que dé respuesta a las nuevas demandas y necesidades de una sociedad en constante cambio

eleaniztasuna bultzatzea eskolan garantizar de igual de educación en la educación el de acceso a la educación

construir reformar y adecuar infraestructuras educativas e impulsar la modernización tecnológica de la enseñanza además de comprometernos a mantener el liderazgo de la formación profesional de excelencia

dieciocho compromisos dieciocho líneas estratégicas asociadas a todos estos compromisos se desarrollaran toda una batería de iniciativas y acciones concretadas y cuyo detalle es público

exigimos la mejor formación posible y ni queremos ni debemos renunciar a ello y eso nos hace fuertes especialmente cuando alguna situación nos puede hacer dudar es cierto que los datos conocidos el pasado mes de diciembre los aportados por la ocde que han provocado esta sacudida fuerte de la sociedad y que está provocando todas estas intervenciones

debemos entenderla como una oportunidad una oportunidad para que todos y todas cada uno desde nuestros ámbitos de actuación y responsabilidad se implique con mayor intensidad si cabe en la educación

pero cuidado no podemos y no debemos caer en el cortoplacismo con la intención de acallar cuanto antes las críticas debemos ser extremadamente responsables

en los últimos meses me he venido reuniendo con los distintos agentes educativos además de otros encuentros llevados a cabo por mi equipo de trabajo nos hemos reunido con agentes de inspección berritzeguneak

y una cosa tengo muy clara tenemos que trabajar de la mano de todos ellos como usted sabe

hacia la obtención de unos buenos resultados en esta evaluación creo que se trata de un hecho cuando menos cuestionable desde un punto de vista pedagógico pero lo cierto es que constata una realidad

en ese sentido euskadi debe saber valorar en su justa medida su influencia en nuestras políticas educativas

impulso o irreal análisis de nuestro sistema educativo tal y como trasladó el lehendakari en el último pleno de control durante treinta y cinco años este país ha creado un sistema de enseñanza del que debemos sentirnos orgullosos

familias comparten con la administración la visión de un sistema que debe seguir generando un compromiso compartido y aplicando medidas de mejora continua y es lo que estamos diciendo una y otra vez

es una obra colectiva que debemos seguir mejorando desde el consenso un consenso que se consigue con realismo con verdad

en los últimos meses y especialmente desde enero de dos mil quince porque sí me gustaría resaltar un aspecto y no es porque lo diga yo lo han recogido decenas de expertos a través de entrevistas o artículos de opinión que hemos podido leer recientemente el resultado de la evaluación

los procesos de cambio requieren su tiempo no son evaluables sin que hayan pasado unos años los mencionados resultados de la ocde que nos han sacudido que nos sitúan

determinado pero ya antes de realizar esa prueba y antes de conocer sus resultados desde el gobierno vasco ya habíamos puesto sobre la mesa numerosas iniciativas que deben ser tenidas en cuenta

en los que ya como primera medida se aumenta el número de horas de ciencias dicho currículum se puso en marcha justo en el curso dos mil quince dos mil dieciséis antes de conocer los resultados de la evaluación pero después de haber sido realizada y el incremento de horas en ciencias era un treinta y tres por ciento

internacional una evaluación propia de nuestra comunidad autónoma censal y cuyos datos se presentaron un año después se plantearon toda una serie de medidas que han sido recogidas en un plan de mejora un plan de mejora del sistema educativo de la comunidad autónoma del país vasco medidas puestas en marcha a partir del mismo curso en que se realiza la evaluación vamos aplicando continuamente medidas de mejora no debemos olvidar que la evaluación pisa dos mil quince se realiza antes de la publicación de los citados decretos como acabo de decir

y que desde el departamento se van adoptando medidas de mejora continuamente nire agerraldian aurrera eman beharreko ekimen batzuk aipatu nituen

es ofrecer al profesorado las herramientas necesarias para ayudarles en la formación permanente

educación es en definitiva el esfuerzo de todo un equipo eskerrik asko uriarte andrea bengoechea andrea zurea da hitza

en diciembre como usted ha dicho y la vida pasa y las cosas suceden y cada vez los escenarios son más evidentes y entonces bueno pues ya que íbamos a hablar de educación me he lanzado yo pero tiene razón tiene poco que ver hay una cosa que ha dicho usted con la que no estoy de acuerdo y es que

los que precipitan toda esa inquietud eso no es exacto me remito

sabe yo le dije una vez que la política es muy cruel porque nos pagan no por trabajar porque yo creo que usted trabaja

infatigablemente yo recuerdo una vez que me dijo que le habían nombrado en diciembre de dos mil doce no se me olvidará eso que me dijo y que desde entonces no había parado de trabajar pero el problema es que a los políticos

por acertar y eso es muy cruel nos pagan por acertar entonces usted aquí me ha hablado de cosas de las que hemos hablado muchas veces pero sabe el problema que yo creo estas palabras

aniztasuna equitativo inclusivo las hemos utilizado tantas veces que ya es como si

significado necesitaríamos quizá encontrar conceptos nuevos porque son palabras

a gastadas y yo creo que la situación requiere una vez se lo pedí

nuevo y poner los pies en el suelo y reconocer los problemas que tenemos

creyendo antes que iba a contestar el señor lehendakari me dirigí a él aquí tenemos problemas bastante más profundos que sencillamente lo que se llaman los resultados académicos tenemos una división social bastante importante sobre lo que debe ser la educación y por eso yo

vamos a ver qué nos preocupa a nosotros ahora y sabemos que usted está trabajando para eliminarlo pero es que el problema es que tenemos que acertar

yo creo que se ha dado cuenta porque no es una lectura que normalmente hagamos que en los informes pisa nosotros ocupamos un lugar

pero si dividimos los resultados del informe pisa en franjas

del índice socioeconómico cultural es decir comparamos aquí a los estudiantes que estén en un nivel cuatro lo pongo así

es que estamos los últimos que no nos oiga nadie nosotros conseguimos los resultados que conseguimos

un índice social y económico y cultural más alto pero si lo loncheamos hacemos franjas estamos los últimos

no lo quiero decir porque la educación vasca nire hezkuntza da ere

orduan niri pena ematen dit benetan que esto sea así verdaderamente pero lo es eso nos preocupa nos preocupa que estemos bastante lejos de los objetivos

de la capacitación en inglés nos preocupa mucho la fp dual porque en la fp dual resulta que se coloca

es una maravilla pero hay ofertas que tenemos de trabajo que no llenamos por ejemplo lo dije alguna vez el manejo de robots que es fundamental en este momento y nos preocupa mucho la fp dual nos parece que esta poco dotada

y el presupuesto se mantiene eso quiere decir que por joven cada vez tenemos menos dinero independientemente de que lanbide aporte y de que la empresa aporte

sobre todas esas cosas creo que tenemos que hablar en diálogo de buena voluntad y llegar a acuerdos eskerrik asko

señora bengoechea por empezar por lo concreto y luego voy yendo a lo más global

sea competencia directa de educación

es el índice de la situación de las familias usted me habla de pisa de los resultados de pisa también le he dicho en mi primera intervención y lo he dicho en otras ocasiones que a pisa

son tres competencias no es la fotografía de nuestro sistema educativo nos habla del inglés yo creo que ayer ya se habló suficientemente del inglés es decir según qué referencia queramos

bueno podremos seguir hablando y discutiendo yo creo que es un tema que tenemos todavía ahí encima de la mesa y nos habla del fp dual señora bengoechea la fp dual me ilusiona que esté preocupada por la fp dual pero yo creo que ya se lo he explicado

somos referentes somos referentes no aquí en el estado somos referentes en europa ayer mismo hemos estado presentes en bruselas porque nos han llamado como referente en todo europa para explicar cuál es nuestro modelo cuál es nuestro modelo de fp por lo tanto yo creo que

estamos orgullosos seguimos trabajando y compartiremos todo lo que haya que compartir pero también como ya le he explicado en distintas ocasiones en la fp dual no es cuestión de que nosotros invirtamos más

es la inversión que realicen las empresas y es la implicación y la posibilidad de que las empresa

y hay que trabajar de la mano continuamente con ellos por lo tanto no es una cuestión pongan ustedes más dinero y pongan así más alumnos en las empresas eso no es así no es de inmediato también usted aludió ayer y esta mañana ha aludido también al cambio de paradigma

usted dijo que había que hacer una reflexión sobre el cambio de paradigma que había que definirlo

no se define es lo que está ocurriendo es lo que está ocurriendo en europa es lo que está ocurriendo globalmente es un cambio que se está produciendo y al que no podemos dar la espalda el aprendizaje por competencia supone activar nuevas formas de intervenir con el alumnado para que partiendo del conocimiento más conceptual de eso se trata absolutamente necesario y básico vaya desarrollando habilidades a través de procedimientos y estrategias que le permitan dar una respuesta adecuada ante determinadas situaciones que superan un binomio previamente establecido

no se concibe sin la evaluación y también una evaluación por competencias este cambio de paradigma supone que hay que adaptarlo a nuestros centros este cambio tiene que estar

de los y las docentes de las familias pero también de los agentes educativos y de las distintas instituciones o asociaciones

tiene por objetivo de llevar al aula el proceso de aprendizaje por competencias conseguir un desarrollo las competencias tanto transversales

hacer y emprender aprender a vivir juntos así como las disciplinares también competencia en comunicación lingüística matemática científica tecnológica social artística

estamos trabajando arduamente para llevar todo esto al aula y para eso

podemos hablar largo y tendido hemos hablado de cómo lo hacemos y después también

y nos planta con seis líneas estratégicas de intervención que yo creo que son las líneas en la que todo el mundo estamos de acuerdo hablamos de formación de la comunidad educadora

educación plurilingüe materiales didácticos y tecnologías de la información

yo creo que estamos todos de acuerdo estamos poniendo las herramientas estamos trabajando y lo que necesitamos es que todos

el decreto que por suerte ayer el congreso

para atrás utiliza la sentencia europea como excusa en nuestra opinión para atacar a uno de los últimos sectores obreros que mantenían unas condiciones de trabajo dignas y estables mi pregunta registrada hace un mes

queríamos saber qué van a hacer ustedes qué va a hacer este gobierno para impedir que esto suceda también a las y los trabajadores que trabajan en la estiba en euskadi

de partido en el congreso de los diputados al dar la espalda y dar una patada a este conjunto de trabajadores y apoyar el decreto del partido popular
no obstante supongo que querrán responderme eskerrik asko hernández jauna lehendakari jauna zurea da hitza

por parte del lehendakari y del gobierno dejar clara que la titularidad la gestión y la potestad regulatoria de los puertos ubicados en euskadi es competencia del gobierno vasco excepto en los puertos de bilbao y de pasaia ambos son todavía de titularidad estatal y seguimos demandando su transferencia

que el gobierno vasco ha mostrado sus reticencias en relación a varios aspectos de la reforma legislativa estatal propuesta por medio

subrayado especialmente el impacto negativo que se deriva de un eventual conflicto laboral sostenido en el tiempo y por eso el gobierno exhorta a los agentes implicados públicos y privados a tender puentes de diálogo y consenso en la regulación y desarrollo de esa actividad siempre desde el respecto a las reglas generales establecidas en materia de libre

acatando así mismo la sentencia a la que usted aludía del tribunal de justicia de la unión europea somos conscientes de la complejidad de esta cuestión lo somos

de hecho se han propuesto acuerdos para la continuidad en el empleo

y las ayudas a las trabajadoras y trabajadores portuarios creo que va a ser muy difícil conseguir mejores acuerdos que los que ayer se proponían pero

el objetivo por lo tanto para nosotros es mejorar la competitividad de las dársenas portuarias y del sector

y en este sentido el gobierno vasco va a hacer todo lo que esté en su mano para fomentar la creación de empleo

corta y pega más o menos de la respuesta que me han dado ustedes a una pregunta parecida que les he hecho por escrito

no es de recibo que usted apele aquí a los agentes sociales que exhorte a la negociación a los agentes sociales y ayer

cuando no ha habido todavía acuerdo entre los agentes sociales y cuando hay todavía tiempo para el acuerdo no tenían ninguna necesidad ustedes ayer de apoyar

eso va a llegar a buen puerto entonces nosotros nos preguntamos a qué se debe que ustedes ayer apoyasen al partido popular luego les fastidia que en otra intervención

les diga que sus nuevos socios son el partido popular queda evidente que tienen ustedes un nuevo compañero de viaje que es el partido popular porque ayer no tenían ustedes ninguna necesidad de haber apoyado ese decreto prácticamente en solitario sin el partido popular y sus socios tradicionales a parte del partido popular y sus socios tradiciones fueron ustedes los únicos que apoyaron ese decreto

hay margen para negociar y por lo tanto no tenían ninguna necesidad para nosotros lo que está pasando con este decreto está muy claro se está pretendiendo

europea para atacar a un sector trabajador que mantenía unas buenas y estables condiciones de trabajo y además en un sector que mantenía beneficios es la vieja fórmula de margaret thatcher

a un sector con buenas condiciones nos han dicho a todos que eran unos trabajadores privilegiados porque ganaban no sé cuánto porque trabajaban no sé cuantas horas etcétera para luego poder meterles mano por eso nos parece que ustedes utilicen como moneda de cambio las condiciones de trabajo de los trabajadores no sabemos qué es lo que han conseguido del partido popular apoyándoles pero nos parece grave y nos parece grave también que en su respuesta por escrito

aquí que es la mejora de la competitividad de las dársenas y en esa respuesta que nos han dado por escrito dice que esto tiene que hacerse también aumentando las horas de trabajo

y carga un barco no sé si usted saben lo que puede suponer estar ocho nueve o cuando las estén si esto es así diez horas haciendo ese tipo de trabajo nosotros lamentamos mucho que ustedes hayan apoyado ayer al partido popular porque no tenían ninguna necesidad de hacerlo a no ser que efectivamente

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mire señor hernández yo no sé dónde quedan para usted y para ustedes

justicia de europa no sé dónde quedan para ustedes en todo lo que pueda ser la contextualización de una negociación y de un diálogo

el tener que contemplar esa negociación en virtud de lo que es una sentencia del tribunal de justicia de europa las evidencias a las que usted se refiere en cuanto a compañeros de viaje es mejor fijarse en las evidencias de las consecuencias

para qué o interpretar quiénes son los socios en cada momento porque aquí socios es partido nacionalista vasco y partido socialista de euskadi para un programa de gobierno compartido señor hernández

a los derechos laborales de los trabajadores del sector de estiba y las decisiones del tribunal de justicia europeo en orden a favorecer la competencia en el sector

todo de nuestra parte para contribuir en la búsqueda de una solución satisfactoria para todas las partes y en este sentido creemos que es necesario favorecer la estabilidad laboral mediante la aplicación de indemnizaciones en los casos de los empleos no subrogados y ampliar las ayudas en términos de prejubilaciones para las personas afectadas la vía es el diálogo entre los representantes sindicales la patronal del sector y la administración española

y la confianza de la ciudadanía para con las instituciones y parece de sentido común que siendo

y la confianza a nadie ese le ocurría tener como director de presupuestos a una persona sobre la que la fiscalía investiga un presunto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos

que no venimos hoy ni no queremos que la respuesta de este gobierno hoy se centre en el estado de las causas si se ha abierto causa oral

tampoco estamos hablando sobre si la comisión de ética ha actuado en base a los establecido en el propio código o

código de conducta ni queremos que nos deleite con una amalgama de fechas para intentar hacer creer que el gobierno ha hecho todo lo que está en sus manos askoz ere sinpleagoa da kontua

hitzez hitz esaten du que a la vista de las circunstancias en las que se ha producido la declaración

el autor de la consulta puede continuar en el ejercicio del cargo que ocupa hasta que en su caso

no la estamos poniendo en duda legalmente en términos legales ni mucho menos cuestionamos su derecho a la presunción de inocencia faltaría más lo único que décimos es que en términos éticos

respecta por lo tanto ustedes adoptando una medida tan laxa

todo sea dicho no están actuando con seriedad ni con rigor seriedad y rigor señor erkoreka porque

es autoenmendarse en su totalidad su propio código ético y me gustaría

a una pregunta que a mí me parece que es de total sentido común

podrían entenderla aunque sea como medida cautelar como medida preventiva por precaución ustedes contratarían como guarda forestal a una persona que está siendo investigada por haber quemado bosques

ni antes ni ahora vamos a aceptar ningún tipo de medida de censura en los medios públicos

el contrato programa es claro en el compromiso de contribuir a la convivencia la pluralidad de opiniones y la cohesión social gobierno parlamento

contamos con mecanismos de control para garantizar el estricto cumplimiento de estos compromisos eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna urruzuno jauna zurea da hitza

las explicaciones ofrecidas por e i te be me parecen por lo tanto necesarias acertadas y suficientes yo he dado esta cuestión por zanjada

lo importante es para mí el acuerdo alcanzado en esta cámara para poner en marcha la ponencia para la reforma de e i te be desde el consenso

empezar a entrar en un terreno de deslinde de cuál es lo humor o lo humorístico

porque pensaba encargar para hoy una camiseta contra garoña

y la importancia que tiene no incurrir en el consumismo de camisetas

para no ofender a nadie así que me la pongo eso sí

para repartir pero bueno no nos quedamos ahí

lo que le preocupa es a quién se adjudican las obras del tav

langabetuen ehuneko berrogeita zazpia señalaba de la rica que pese a tener unas tasas de desempleo más bajas que en otros sitios del estado

la propia de la rica consideraba apremiante que se acelere la puesta en marcha de medidas de orientación integral incluyendo la formación de este colectivo para conseguir revertir

no son válidas señora artolazabal drama baten aurrean gaude

y además recortamos el sistema de protección un binomio perfecto para un guion de película

lo que pasa que ese guion es una realidad en esta comunidad autónoma porque estamos llevando a esas personas a la desesperanza horregatik galdera zuzena

comparto con usted que la atención a las personas paradas de larga duración es un gran reto que tenemos ya que constituye uno de los problemas más graves y difíciles que ha causado la crisis económica

en la pobreza y en la exclusión social la cronificación de las personas desempleadas es una de nuestras mayores preocupaciones y para evitar esa situación y buscar

la prolongación de esta situación genera especial dificultad para reengancharse al empleo entre los factores que afectan a la salida hacia un empleo

principales determinantes junto a ello la demanda de perfiles con mayor cualificación por parte de las empresas supone un

por tanto una de las prioridades en la lucha contra el desempleo consiste en evitar su cronificación y el desempleo crónico tiene importantes consecuencias para las personas como problemas de autoestima riesgo de exclusión social menores expectativas de acceder a un empleo

ya que puede producirse una mayor desigualdad social por estas razones la actuación de apoyo a las personas con especiales dificultades de acceso al empleo

poniendo a su disposición el conjunto de recursos necesarios para posibilitar su regreso al escenario laboral desde ese proceso planificado y ordenado conseguiremos aumentar las posibilidades de reincorporación de estas personas al mercado laboral alguna de las claves que deben seguir este tipo de intervenciones ya están recogidas en la estrategia vasca del empleo y son en primer lugar la adopción de un enfoque personalizado que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada colectivo y persona cada situación y cada persona precisan instrumentos de apoyo diferentes y en diferentes momentos por lo que una definición adecuada

la recualificación que también se muestra como una de las principales exigencias

es una de las iniciativas que tenemos que llevar a cabo sobre todo en el caso de personas con escasa formación o que por diferentes razones por ejemplo haberse dedicado al cuidado doméstico o de personas dependientes han estado mucho tiempo alejadas del mercado de trabajo

ha de acabar tanto con las competencias específicas como con otras competencias transversales

a un empleo asimismo y dentro de estas claves unos valiosos instrumentos

y por su utilidad para estas personas son las empresas de inserción que ya pueden constituirse en un puente valioso entre la fase de recualificación y el acceso

existen empresas de inserción dedicadas a colectivos específicos y hay muchas que marcan entre sus principios ese objetivo de recuperar para el mercado laboral a esas personas paradas es fundamental seguir apoyando estas iniciativas y por último otra clave es el mantenimiento y desarrollo de incentivos a la contratación especialmente es estable de estas personas con especiales dificultades de acceso al empleo las recomendaciones de la unión europea para la definición de las medidas a desarrollar por la atención a las personas desempleadas de larga duración definidas en la misma línea la recomendación está dirigida

un plan concreto y personalizado a fin de determinar sus necesidades y su potencial y ofrecerles lo que la comisión llama un acuerdo de integración laboral pues bien

ya desde el dos mil catorce existe un servicio de orientación especializada para colectivos con especiales dificultades en la inserción laboral

han recibido un servicio determinado el número de esas atenciones

de las cuales el setenta y ocho por ciento han sido referidas a la orientación

entendiendo que en esta situación se encuentran aquellas personas que llevan más tiempo en el desempleo

con ellas para poder conocer más detalladamente su cualificación para el empleo así como sus necesidades entre ellos se encontraba el colectivo de mujeres

habían trabajado durante periodos inferiores a doce meses conocer la cualificación y experiencia de todas estas personas en el empleo es fundamental

sus competencias gestionar y facilitar los recursos formativos más ajustados a su realidad por tanto

reciben un tratamiento personalizado donde se identifican los recursos y las necesidades que tienen para así iniciar lo que en lanbide recibe el nombre de acuerdo personal de empleo

incluir una tutoría el apoyo en la búsqueda de empleo y formación complementaria así también como la ayuda en la solicitud de la renta de garantía de ingreso al mismo tiempo gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre el servicio vasco de empleo con más de ciento cincuenta ayuntamientos de la comunidad autónoma en el marco de los convenios de inclusión activa

para garantizar la coordinación entre diferentes ámbitos de la administración en la orientación y seguimiento de estas personas desempleadas esto no es más que el inicio de aquellas políticas que permitan el abordaje integral de las personas a fin de garantizar la continuidad y la coherencia del servicio

de esta forma desde la administración vasca desde el gobierno ofrecemos un servicio personalizado continuado en el tiempo combinando con la formación compartido con otros sistemas

el problema es complejo y por tanto la respuesta no puede ser única en estos momentos el departamento de empleo y políticas sociales se encuentra inmerso en la definición

de empleo dos mil diecisiete dos mil veinte va a ser una herramienta fundamental para que reduzcamos la tasa de desempleo por debajo del diez por ciento y es una tarea

las medidas prioritarias que estamos definiendo en ese plan están dirigidas a promover y posibilitar el acceso al mercado de trabajo

y tal como lo recogemos en el programa de gobierno el empleo va a ser nuestra prioridad eskerrik asko eskerrik asko artolazabal andrea kortajarena andrea zurea da hitza

ante un discurso de larga duración como el desempleo ze egia esan sentsazioa dut

nos han dejado solos nos han dejado solas les estamos dejando solos bakarrik geratzen ari dira pertsona hauek eta ezin dugu etsitu

yo también comparto la idea de que tenemos que evaluar las políticas que ponemos en marcha porque además

creo que el dato del paro del mes de febrero de este año nos daba un indicador

que motivar a la hora de seguir trabajando porque ya en ese dato de desempleo se demostraba o había indicios de que los parados de mayores de cuarenta y cinco años empezaban a incorporarse al mercado laboral por tanto sí que es verdad que hay que seguir haciendo cosas pero también

funcionan es que ese tipo de colectivos

cuáles son las personas porque las recetas no son iguales para todos el colectivo de personas de más de cuarenta y cinco años y de larga duración junto con las mujeres y los discapacitados es algo que tenemos muy presente aparte de la juventud que para eso

otra de las iniciativas cuando me dice que somos autocomplacientes

lo que sí que tenemos que poner en valor es el resultado y el trabajo y el esfuerzo que este gobierno junto con esta cámara y el resto de la sociedad pone para evitar que estas situaciones

y sí que estamos poniendo iniciativas innovadoras o por lo menos nuevas como usted ha resaltado con la puesta en marcha de este observatorio de prospectiva que lo que va a hacer es intentar conciliar las necesidades que estas empresas tienen en nuestro tejido empresarial con los

incluidos los de larga duración tenemos que poner en marcha desde el año dos mil quince las distintas convocatorias de las ayudas locales de desarrollo dotadas con más de veinte millónes de euros tienen establecido como colectivo prioritario para las contrataciones realizadas tanto por empresas como por las propias entidades locales o forales aquellas personas en situación

entre las que se destacan las que llevan más de doce meses en situación de desempleo dentro del último año y medio esta iniciativa se pone en marcha sin esperar a que estas personas lleven más de dos años

en nuestras iniciativas no solo contemplamos las especiales dificultades de la población a la que usted se refiere sino que también para nosotros el concepto de persona desempleada de larga duración es objeto de una detallada atención y desarrollo y no en vano se trata de quienes están padeciendo la crisis

tengamos más presentes para poder presentar iniciativas con el objetivo de que vayan accediendo al mercado laboral con esta iniciativa promovemos que las empresas faciliten esa incorporación y también

un desarrollo profesional importante pero que por una situación complicada han tenido que quedarse en el ámbito del desempleo puedan acceder al mismo

este gobierno se ha comprometido a presentar en el primer semestre del dos mil diecisiete un programa marco de empleo y de reactivación económica donde el plan estratégico de empleo

de llevar a cabo debemos incluir medidas a favor del empleo juvenil

de impulsar los planes locales y comarcales para priorizar las actuaciones dirigidas a favorecer la empleabilidad de aquellos colectivos que tienen mayores dificultades en la inserción laboral

en la que determinábamos cuales eran las iniciativas y las acciones que en el ámbito de los parados de larga duración llevábamos a cabo y vamos a llevar a cabo

y que a través de esas experiencias temporales de trabajo se potencia su cualificación su competencia y su motivación insisto

a personas que pertenezcan a alguno de los siguientes colectivos mayores de treinta y cinco años mayores de cuarenta y cinco

personas desempleadas de larga duración al menos un cuarenta por ciento

y concluyo el empleo es nuestra prioridad nuestro eje básico de actuación es el trabajo y gestión para conseguir un mejor y

señor arriola estos días de atrás mientras preparaba esta interpelación he tenido dudas de como presentar este tema de la economía circular ante el pleno porque

a pesar de que es un tema crucial desde el punto de vista de elkarrekin podemos para la economía vasca por eso creo que es obligado comenzar explicando que la economía circular

las famosas tres erres de reducir reutilizar y reciclar nuestros residuos solo que ahora hay un montón de

organizando charlas para explicar el concepto porque parece por fin que ahora los gobiernos se han dado cuenta de algo que el movimiento ecologista lleva explicando desde hace más de cuarenta años a quien quiera escucharlo

tiene entre otros muchos defectos tres puntos débiles en cuanto a su sostenibilidad el primero es que nuestras economías producen una ingente cantidad de residuos debido por un lado a un consumo desmedido de los productos de usar y tirar y también a que se venden productos con una vida

otros nuevos productos el segundo punto débil es que nuestras fábricas también las vascas utilizan las materias primas de forma muy poco eficiente

y el tercer punto débil es que si continuamos con este ritmo de producción y consumo algunas de esas materias primas van a escasear y otras se van a encarecer como de hecho ya lo están haciendo lo cual va a ir en perjuicio de aquellas economías que generen más residuos

primas de una forma menos eficiente por eso la comisión europea consciente de estas debilidades lleva varios años preocupada por los posibles efectos negativos sobre la economía europea que pudiera tener la escasez de algunas materias primas esenciales

tanto la comisión europea como algunos gobiernos se han dado cuenta de que el futuro de nuestras economías pasa necesariamente por desarrollar tres líneas de trabajo la primera fabricar productos más duraderos y de mejor calidad y hacer frente

prolongar la vida útil de los productos procurando que existan actividades y repuestos que permitan su reparación así como su reutilización por parte de otras personas y la tercera línea de trabajo es la de reciclar los materiales residuales que se generan en nuestra sociedad para lo cual es preciso

y pasar a percibirlos como materias primas valiosas que pueden generar riqueza y empleo hasta llegar incluso al objetivo del residuo cero porque así es

incineración solo crea uno pero es que además el reciclaje permite recuperar materias primas inexistentes en un país como euskadi como por ejemplo los metales

en las calles de nuestras ciudades muchas personas en riesgo de exclusión y esa minería urbana es más rentable y menos contaminante que la tradicional y sin embargo aquí en euskadi la tendencia que siguen nuestras administraciones es precisamente la contraria

y por eso buscamos soluciones rápidas y contundentes como la incineración sin caer en la cuenta de que cada kilo de basura que entra en una incineradora es un kilo de riqueza que estamos destruyendo

y digo bien son materiales que destruimos porque la valorización energética

no solo no produce energía sino que la consume quemar una tonelada de papel como este exige gastar seiscientos veintiséis calorías

un árbol en esta hoja de papel basta con aplicar el primer principio de la termodinámica para darse cuenta del fraude

por otra parte el martes pasado el parlamento europeo aprobó un informe en el que se hacen una serie de enmiendas a la directiva marco de residuos y entre ellas se propone incrementar para dos mil treinta

y el objetivo de reciclaje de los residuos de envases hasta un ochenta por ciento

y sin embargo los grupos que apoyan al gobierno no han podido resistirse a la tentación de citar en su acuerdo de legislatura la necesidad de favorecer la economía circular y leo textualmente

incentiven la reutilización el reciclaje y la valorización de los residuos así como a través de instrumentos de fiscalidad verde en coordinación con las diputaciones forales ahora bien en la práctica cuando ha llegado el momento de echar números la apuesta por la economía circular del gobierno

tanto ruido para tan pocas nueces de ahí mi interpelación

reciclaje y compostaje que nos van a llegar en breve desde la unión europea cómo vamos a adaptar una economía como la vasca a los principios de la economía circular si nos estamos dedicando a quemar
la riqueza que contienen nuestros residuos muchas gracias eskerrik asko becerra jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

gracias presidenta dentro de la estrategia europa dos mil veinte

principales es caminar hacia una europa que utilice eficazmente los recursos dentro de ella se enmarca el concepto de economía circular que pretende cambiar la actual economía lineal de extracción de recursos fabricación utilización y eliminación por un nuevo modelo circular de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales energía y residuos

es la mayor eficiencia en el uso de los recursos uno de los principales hitos de la promoción de este concepto fue la adopción

de un paquete de medidas del denominado plan de acción de la unión europea para la economía circular que pretende

hasta su residuo y su reintegro al mercado como una nueva materia prima

el crecimiento económico y la inversión se actúa también sobre el cambio climático y el medio ambiente en este sentido el veintiséis de enero

ha realizado el primer informe sobre la aplicación del plan de acción y de economía circular el cual incluye orientaciones a los estados miembros sobre la transformación de residuos en energía y propone una mejora de la legislación

las líneas marcadas por la unión europea respecto a los residuos fijan unos objetivos claros de reducción

que mi departamento va a impulsar para alcanzarlos en euskadi para ello hemos fijado una estrategia que no se limita solo a imponer un canon de vertido para el depósito de los residuos en el vertedero sino que pretende a partir de la situación actual

que integre las distintas actuaciones en una misma línea que implique a todos los agentes tanto poderes públicos como entidades sociedades privadas y ciudadanos

las líneas de actuación del departamento van a seguir estos ejes uno la promoción la reutilización y el reciclado desde una perspectiva real aplicando

ihobe dos fomentar la colaboración público privada

de forma que se evite el depósito en vertedero y permita su reintroducción

para evitar su vertido y promover su reaprovechamiento cuatro promover la contratación pública verde y cinco estudiar y desarrollar la fiscalidad verde respecto a la primera línea de promoción promover la reutilización

a las empresas para que desarrollen productos y servicios de mayor valor añadido y cuenten con procesos más eficientes de manera que les permita mejorar su competitividad

de materiales que utilizan para ello desde ihobe estamos trabajando

orientando a apoyar la pequeña y mediana empresa clave dentro del tejido empresarial vasco en un centro que aglutina a cincuenta empresas

es la formación y capacitación de su personal para lanzar proyectos técnicos realizados con criterios de coinnovación y servicios que mejoren su posicionamiento en el mercado

se logró documentación y procedimientos que puedan aplicarse a las empresas vascas y que tienen un valor importante desde el punto de vista de los objetivos que queremos alcanzar también se trabaja desde ihobe

jóvenes en proyectos de ecoeficiencia de diversa índole a través de colaboraciones con distintas universidades para promover la creación de empleo en el sector de la ecoinnovación y además participamos

respecto al fomento de la colaboración público privada la idea es crear un vínculo entre las empresas de forma que los productores de residuos de determinados sectores industriales

una infraestructura que permita la conversión de aquellos en materias primas o productos para otro tipo de empresas se abre de este modo

alrededor de los residuos que ayudará a crear empleo en este sentido las actuaciones pasarán por la búsqueda de tecnologías emergentes

la línea de proyectos de demostración economía circular de ihobe una convocatoria de ayudas cuyo objetivo es crear

realizando pruebas industriales o preindustriales que confirmen la viabilidad técnica económica y ambiental de alternativas innovadoras

a la remanufactura y reutilización de plásticos

promover desde la dirección de administración ambiental la actualización de las autorizaciones ambientales integradas de acuerdo con las mejores técnicas disponibles que se marquen desde la unión europea la participación activa de representantes de la dirección de administración ambiental en los distintos comités europeos para la elaboración de nuevas normas y su posterior comunicación

a los distintos sectores el desarrollo de guías y especificaciones técnicas desde ihobe este año concretamente sobre bombas de alta eficacia

recuperación de calor residual en hornos tecnologías

y control de procesos líneas de subvenciones anuales a ayuntamientos y empresas desde las direcciones de patrimonio natural y cambio climático y desde

que incluirán un apartado especifico para residuos y proyectos vinculados a la economía circular o con efectos en este ámbito lanzamiento de proyectos tractores

vamos a estudiar varias posibilidades

hasta el fomento del uso de algunos residuos para otros sectores concretamente

y una instrucción técnica para residuos de construcción y demolición además teniendo en cuenta el complejo proceso de aprobación de este tipo de normas se avanzará en el estudio de otras líneas de residuos como puede ser tierras limpias de excavación

procedentes de la quema de biomasa lodos de destintado y carbonato

de acería todo ello con la finalidad de

resulta necesario crear un mercado que demande los nuevos productos surgidos al amparo de la economía circular y en ella

como consumidor y por ello vamos a fomentar la compra pública verde hasta ahora muy poco desarrollada y continuaremos trabajando para facilitar su aplicación

en este ámbito desde ihobe se va a estudiar y elaborar cláusulas de tipo de compra cláusulas tipo de compra verde que facilitan

en los pliegos de contratación de productos y de servicios y promover así

de residuos dando ejemplo nuestro departamento va a ser el primero en incorporar criterios ambientales

un plus en las obras y servicios que promueva y liderando el modelo de administración ambientalmente responsable que debe entenderse al resto del sector público

también viene derivada desde la unión europea

y las haciendas forales de euskadi muchas gracias eskerrik asko arriola jauna becerra jauna zurea da hitza

yo señor arriola ya conocía parte de estos planes que usted me ha presentado

conozco el trabajo que está haciendo ihobe en materia de eficiencia y de ecodiseño y es un trabajo importante que se hace de la mano de la empresa vasca y que tiene su recorrido también conozco lo que ha hecho ihobe históricamente en tema de compra pública verde no es algo novedoso que nos presente usted ahora

me alegro que por fin se pongan a ponerlo en marcha pero a lo que yo me refería en mi intervención es a que ahora mismo

está en los residuos urbanos es en los residuos urbanos

estamos haciendo peor las cosas como país y es en los residuos urbanos donde ya le pedí a usted en su primera comparecencia en comisión para explicar los planes de su departamento

afrontar su responsabilidad y su competencia en materia de coordinación de los diferentes planes de residuos de los territorios históricos porque ahora mismo lo que tenemos en euskadi es

en araba la mayor parte de los residuos van a vertedero en bizkaia los quemamos y en gipuzkoa los vamos a quemar y eso va radicalmente en contra

eso significa que todas las inversiones que se están haciendo en ese sentido son erróneas equivocadas y además van a tener graves repercusiones para la economía vasca

de gestión de residuos urbanos nos están pidiendo en la unión europa que

para boicotear determinados sistemas de recogida selectiva no creo que esos índices de recogida selectiva vayan a mejorar porque hace años que no se hace ni una sola campaña para fomentar la separación en origen en materia de reciclaje nos van a pedir

ahora mismo una cuarta parte de los envases que van al contenedor amarillo acaban incinerándose

y no se está diciendo nada al respecto si realmente hay un espíritu y un interés por fomentar el reciclaje y la reutilización

para implantar un sistema de retorno de envases eso sí es efectivo para reducir la cantidad de envases y en tercer lugar nos van a pedir que reduzcamos el vertido

donde nos encontramos con quien nos dice usted vamos a implantar un canon de vertido está bien implanten también un canon contra la incineración porque la incineración también nos impide cumplir los objetivos de la unión europea además la incineración nos provoca indirectamente que incrementemos las cantidades de vertido fíjese

en su diseño hace veinticinco años qué tiene ahora mismo mallorca pues una noticia del mes pasado dice medi ambient el departamento de medio ambiente alerta que la capacidad del depósito de cenizas se está agotando sin solución

el treinta por ciento de las basuras que se incineran se convierten en escorias que tienen que ir a un vertedero con lo cual esa política que han vendido ustedes en gipuzkoa de que se acabaron los vertederos es radicalmente falsa y vamos a seguir incrementando la cantidad de vertederos de este país ya no para no meter basura sino para meter las escorias de la incineradora y esto nos pone radicalmente

por lo tanto lo que sí le pediría como gobierno es que de alguna manera por la responsabilidad que nos compete frente a la economía vasca por fin empecemos a fomentar el reciclaje y la reutilización porque

tiene necesidad de ciertas materias primas que solo podemos encontrar ahora mismo en los residuos y le voy a leer en dos mil diez la comisión europea advirtió de la escasez de catorce materias primas minerales

productos de alta tecnología como teléfonos móviles módulos fotovoltaicos baterías de ión litio o cables de fibra óptica que nuestra economía está fabricando faltan antimonio berilio cobalto espato flúor galio germanio grafito indio magnesio niobio volframio

solo se consiguen con el reciclaje por lo tanto le pediría que modifiquen las políticas de su gobierno porque el interés de la economía

por encima de cualquier otra consideración de tipo político y económico gracias

vale de acuerdo pero me va a escuchar a mí porque le voy a responder también a lo que era la pregunta

a lo que usted ha dicho pero voy a responder a lo que me decía la pregunta dice usted que solamente hay una partida de trescientos cincuenta mil euros en el departamento frente a las necesidades derivadas de la economía circular y la verdad es que en fin

que se refiere a economía circular en una dirección

del departamento de medio ambiente que se refiere a gestión de residuos pero

para nada en cuenta desde el punto de vista de lo que son las partidas y la economía

desde ihobe lo reconoce aquí en la tribuna pero parece que no cuesta dinero efectivamente cuesta y mucho y otras actuaciones también que desde el departamento se desarrollan relacionadas con la economía circular y no solamente en lo nuestro sino en otros departamentos

esto es algo que impregna al conjunto de la labor del gobierno en lo que hace referencia exclusivamente al departamento de medio ambiente y a ihobe

relacionadas con la economía circular muy directamente como es la línea de ayudas para proyectos de demostración en economía circular

estudios de actuaciones normativas en materia de economía circular gestión de residuos trescientos cincuenta mil que es a la que se refería usted

proyecto de economía circular que se financian con cargo a las partidas de subvenciones ayuntamientos

en este presupuesto y también con subvenciones a empresas para inversiones un crédito

créditos de pago y compromiso de dos millónes ciento veintiséis mil euros ecoeficiencia y fabricación verde quinientos cuarenta y dos mil euros ecodiseño y basque ecodesign center doscientos cincuenta mil compra de ciento treinta mil proyecto dos mil veinte hamabost mila

de algo más que una partida específica de trescientos cincuenta mil euros

y además como le decía es un compromiso explícito del programa de gobierno y en consecuencia es una política asumida también por el conjunto de los departamentos que conforman el gobierno vasco vamos a ver

el reciclaje y el tratamiento adecuado de los productos derivados en ese sentido de lo que son los residuos

hace referencia y vamos paulatinamente

usted ha utilizado esta tribuna en estos momentos en base a esta interpelación que me ha hecho para hacer un ataque directo a lo que es

de residuos un sistema que lo que pretende es que una vez realizado todo el proceso de recogida selectiva reciclaje utilización etcétera la fracción resto

se pueda también valorizar mediante la generación de energía eléctrica eso es el objetivo de las incineradoras como les llaman ustedes o las plantas de valorización energética

el desarrollo de estos proyectos y me habla usted de la economía circular y

apostar por este tipo de soluciones va en absoluto en contra de lo que son las normativas

yo lo que le puedo decir es que el cierre el cierre

reciclaje reutilización valorización y facción resto eliminación con la conversión en energía eléctrica es

directamente en beneficio de la economía circular porque permite que todo se valorice hasta el último

si el concepto de usted de economía circular es el que las basuras circulen

por todas las carreteras de euskadi y otras comunidades incluso de francia

la convivencia forma parte de los principios generales de la educación que se han plasmado en el modelo educativo pedagógico en el decreto por el que se establece el currículo de educación básica se establece en su artículo dos como principio general las implicaciones y vinculaciones de la convivencia escolar y la promoción de proyectos educativos

desarrollada desde hace tiempo en este ámbito sino que refuerza este planteamiento con la propuesta de las competencias básicas transversales y su necesaria relación con las básicas disciplinares

en todos los ámbitos y situaciones de la vida en situaciones personales y sociales además de las académicas o laborales estas situaciones están muy ligadas a los contenidos de tipo actitudinal

hábitos o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas

sentimientos preferencias valores sobre un determinado objeto persona o situación no se puede hablar de actitudes sin hacer referencia a los valores en los que se sustentan y fundamentan el valor implica lo que se considera apreciable o deseable la actitud se traduce en la disposición estable a actuar en coherencia con el valor

el pasado mes de septiembre se proporcionó a los centros educativos una guía para la elaboración del plan de convivencia del centro

pongan en marcha y evalúen objetivos anuales de mejora de la convivencia el servicio de inspección en este momento está diseñando un procedimiento para supervisar la manera

contribuyen a la necesaria convivencia positiva y a la prevención de los problemas de convivencia y de manera especial del acoso escolar

de forma complementaria la inspección de educación incide en este tema abordando en los centros temas como

destacar los procedimientos que tiendan a la resolución pacífica de los conflictos a lograr la conciliación y la reparación así como directrices para la asunción de compromisos educativos para la convivencia por otro lado activar el plan de acción tutorial como un proceso de ayuda continua y sistemático

y en la medida que los centros tengan que actualizar su rof o reglamento de régimen interno es necesario incidir en la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa

así como el cumplimiento de los deberes por otro lado contamos con un decreto sobre derechos y deberes de los alumnos y alumnas cuyo objetivo es la regulación del marco de convivencia se trata de favorecer positivamente la convivencia y acuerdo con planes que los centros docentes incluyen en sus proyectos educativos

este abordaje educativo es fundamental para desterrar las conductas de ruptura de la convivencia y especialmente el del acoso entre iguales el acoso escolar no es un problema aislado y puntual

por lo que las soluciones requieren los esfuerzos de toda la comunidad escolar este departamento está favoreciendo el desarrollo de proyectos educativos de centro

a las prácticas fundamentadas en el respeto a la diversidad de las identidades culturales de género y orientación sexual

etcétera en este contexto los órganos de gobierno de los centros docentes los profesores y profesoras y el resto del personal están colaborando en la erradicación del maltrato entre iguales siguiendo los procedimientos establecidos comunicando al director o directora para su traslado a la administración educativa cualquier indicio que se observe en este ámbito

funtsezkoa izaten ari da arlo horretan hobetzeko como consecuencia de la implicación de la inspección en este proceso es necesario subrayar que las actividades de sus planes anuales tienen un peso importante las tareas destinadas a garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de la comunidad educativa

al respeto a su integridad física y emocional y a recibir una educación integral en un clima de convivencia positiva

durante el desarrollo de sus planes la inspección está haciendo seguimiento de los casos de acoso escolar o cualquier otra manifestación de conductas contrarias a la convivencia

en los centros de acuerdo con lo indicado en la mencionada guía de actuación y en el protocolo que se incluye en la misma en todo caso

está siendo un elemento clave ante la máxima tolerancia cero al acoso escolar que debe regir en todos los centros educativos de la comunidad autónoma del país vasco

transmitiendo ese mensaje de forma nítida ante cualquier conducta agresiva que se manifieste en el grupo de iguales e incorporar la mejora de la convivencia y el rechazo a cualquier forma de maltrato como objetivo prioritario de todo centro educativo asimismo el acuerdo firmado con el departamento de seguridad se plantea como medida complementaria con la finalidad de favorecer medidas preventivas

y de actitudes contrarias a la convivencia escolar en resumen

poner en marcha los medios a su alcance para prevenir los actos violentos apoyar y promover la presencia de factores positivos o preventivos y disminuir aquellos que alteren la adecuada convivencia y todo ello

se potenciará el trabajo con el alumnado para desarrollar competencias socioemocionales implicando a todos los participantes del proceso educativo

aunque centralizándolo en torno a un plan de acción tutorial individual y grupal

y cuya finalidad primordial será dotar al alumno de las herramientas necesarias para aprender a convivir el plan contra el acoso escolar contempla diferentes medidas y procedimientos además de material didáctico específico para trabajar la convivencia positiva y para facilitar la detección de indicadores de riesgo del ámbito del acoso escolar se estructurarán medidas organizativas que faciliten el asesoramiento especializado a los centros

para colaborar con ellos en la evaluación de la eficacia de las acciones que se desarrollan se impulsarán procedimientos que faciliten que en los centros educativos se trabajen estrategias

para trabajar las competencias socioemocionales y valores de convivencia

en las tutorías grupales formar comisiones de alumnos y alumnas formados en la detección de conflictos y la colaboración en la resolución de los mismos para la mejora de la convivencia

implicar a todos los sectores de la comunidad educativa para que participen en las estructuras y medidas de mejora de la convivencia del centro

desarrollar vías asequibles a los niños y las niñas para poder comunicar las incidencias de acoso escolar y ciberacoso fácilmente campañas de sensibilización acuerdos de colaboración con servicios organismos entidades que puedan contribuir a la mejora de convivencia y la prevención

tratamiento educativo para aquellos casos en que se detecten situaciones inadecuadas en el desarrollo de la competencia para convivir acciones de reparación para aquellos alumnos que hayan podido sufrir situaciones en el ámbito del acoso

o por ejemplo también la inclusión en los planes anuales de objetivos dirigidos a garantizar y o mejorar la convivencia en el centro

y en relación activa es legítimo y loable que los centros busquen las soluciones más adecuadas en su contexto y trayectoria

y vamos a elaborar un plan integral que acoja todo lo anterior más todas las nuevas medidas que acabo de comentar

zurea da hitza muchas gracias señora presidenta consejeras
consejeros señoras y señores parlamentarios buenos días

vamos a seguir hablando de acoso en este caso en la universidad señora consejera ha comenzado

para impulsar la vía de reagrupamiento de los presos

esta campaña está construida sobre los postulados tradicionales de la izquierda abertzale pretende

se identifiquen con esta iniciativa en favor de los presos de eta y tratar de recoger

personales profesionales y laborales de las personas firmantes lo que quiere decir también de los no firmantes que eso es lo grave

como dice la comunicación de los organizadores durante el mes de marzo recogeremos firmas de la comunidad universitaria

a la iniciativa envía un mensaje a una dirección tu nombre tu apellido tu sector

pdi alumnado y centro es decir perfectamente identificadas las personas las que firman

a la vista de esta campaña de identificación de trabajadores en favor de los

solicitamos que la señora consejera nos responda cómo valora

mahaiburu andrea aprovechando esta pregunta del señor barrio y dado que se trata de acciones en el ámbito universitario

para trasladar mi más profunda condena a los ataques que está sufriendo la upv

este mediodía ha tenido lugar una nueva concentración de repulsa horas después de que este mismo parlamento haya acordado una declaración por unanimidad subrayo una vez más en nombre del gobierno vasco nuestro apoyo y solidaridad con la comunidad universitaria

quiero trasladar públicamente desde aquí mi total apoyo profesional y personal a la rectora nekane balluerka

profesorado y estudiantes no lo podemos tolerar

ez du halakorik merezi la comunidad universitaria trabaja por y para el conocimiento su fortaleza radica en el contraste de ideas en el debate y en la reflexión la fuerza y la intimidación carecen de espacio en la sociedad vasca en general y en el mundo universitario en particular

mostré mi esperanza de que hechos similares no se volvieran a producir

el campus de álava sufría un nuevo ataque y horas más tarde ayer mismo una nueva agresión ya vale barrio jauna

gracias presidenta gracias consejera yo no sé si serán personas anónimas

lo que sí que hay señora consejera es una campaña orquestada contra la universidad en diferentes ámbitos y con diferentes expresiones y su prioridad

es proteger a los trabajadores a los alumnos de la universidad del país vasco de las campañas de acoso las violentas

en esa violencia o en la radicalidad y la obsesión es muy grave esta coincidencia de ataques contra la upv acoso a los trabajadores

de huelgas con determinadas expresiones que todos podemos prever todo previsto además

de marzo en lo que es una campaña orquestada auténticamente la violencia por un lado

para dar protagonismo al acoso a la universidad a sus trabajadores a la sociedad en general a través de la universidad las firmas de algunos colectivos

y para presionar a los trabajadores algunos firmarán

firman o para obligar a que firmen algunos y la huelga de la semana que viene lógicamente en esa campaña en este mes

seguir presionando en este caso a los alumnos pero también a los trabajadores y en ese sentido señora consejera algo tendrá que hacer su gobierno

parlamento la condena de ayer y usted en este momento también la condena pero algo tendrá que hacer

de seguridad el lehendakari usted misma medidas para proteger a los trabajadores y a los alumnos de la universidad a esos trabajadores

coaccionados por la campaña por la campaña porque no van a firmar pero van a formar parte de ese fichero activo
saben manejar los violentos muchas gracias y hagan algo por favor eskerrik asko barrio jauna uriarte andrea zurea da hitza

de verdad le preocupa es dar respuesta a los incidentes que se están produciendo en la upv es nuestra prioridad no podemos permitir que hechos como estos se produzcan y que adquieran un tinte de cierta normalidad

y estamos trabajando en estrecha colaboración con la upv las reivindicaciones a título personal y no violentas son una cosa y la agresión y la intimidación son otra cosa bien distinta

el gobierno vasco ha cometido varias ilegalidades se ha saltado sus propias normas en los procesos de licitación a empresas privadas para distintos servicios

el órgano administrativo de recursos contractuales del gobierno vasco

en la resolución del veinte de febrero y en la resolución del dos de marzo del presente ha hecho caso omiso de sus propios acuerdos de sus propias leyes por una parte del último acuerdo regulador de las condiciones laborales de osakidetza firmado en el dos mil ocho cuyo artículo trece

asume el compromiso de no externalizar o privatizar nuevas áreas o servicios dicho acuerdo

ciento seis barra dos mil ocho señor consejero además de presentar un recurso contencioso administrativo

qué piensa hacer para que funcionen la mayoría de los servicios

tiene el consejero un plan b que genere empleo público eskerrik asko uria jauna erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

ilegalidades téngalo usted presente porque se lo repetiré a lo largo de la legislatura

del año dos mil ocho que posteriormente tiene una corrección

donde pone un término muy importante preferentemente con recursos propios

nuestro servicio público de salud no ha cambiado algunos sindicatos

ni siquiera todos los sindicatos pretenden cuestionar el modelo de gestión

se externalizan o no a empresas especializadas pero como decía

y es el más adecuado para garantizar calidad eficiencia y sostenibilidad en definitiva garantizar nuestro sistema sanitario público vasco un modelo basado en la gestión pública que se complementa con provisión externa de algunos servicios no asistenciales servicios que están externalizados en todos los hospitales comarcales de osakidetza le pondré un ejemplo de las ocho organizaciones de servicios que tienen osakidetza en bizkaia de las ocho siete tienen externalizada la lavandería en el caso concreto de la osi uribe en la que se integra el nuevo hospital de urduliz

dónde aprecia su señoría el cambio de modelo en nuestra opinión ni hay cambio de modelo

de nuevas actividades y servicios y por supuesto cumpliremos la ley eskerrik asko darpón jauna uria jauna zurea da hitza

lo dice el órgano administrativo de recursos contractuales que nos han pasado a elkarrekin podemos por la izquierda es usted muy hábil explicando lo que son esas matizaciones y lo que es el modelo gestión más de cuatro hospitales de los que hay

además tenían acuerdos de hacer una lavandería central que ni siquiera lo han cubierto el problema es quién está desprestigiando aquí osakidetza y quién está planteando problemas

los que se saltan sus propias normas los que desprestigian sus propios acuerdos los que desprestigian sus propios procesos de negociación que son complejos de llevar adelante

quien pretendiendo una supuesta reducción de costos jugando a ser gerente eficiente no creen empleo público aparte de las cuatrocientos plazas que se van a crear en urduliz porque el hospital no va a funcionar vacío la administración pública vasca debe dar ejemplo de crear empleo

empleo de calidad no favorecer el empleo precario no es más eficiente el sector privado nada lo demuestra no tiene más calidad que el sector público no existen evaluaciones internacionales contrastadas que lo afirmen las llamadas app asociaciones público privadas están en entre dicho en todo europa que se evalúe el funcionamiento de las externalizaciones realizadas

con los mismos indicadores de calidad con los que evaluamos los servicios prestados

y luego que se comparen y luego hablamos tenemos tiempo señor consejero de hablar de estas evaluaciones no hay atajos para mejorar la gestión hay chapuzas e ilegalidades

en el sector sanitario y en la administración pública vasca consensuando la mayoría de la gestión de nuestros fondos estamos haciendo el verticalista y la chapuza más impresionante

señor uria es normal que le pasen a ustedes por la izquierda el oarc

si se dedican ustedes a desprestigiar a los trabajadores de las empresas

a los trabajadores de las cocinas externalizadas de las limpiezas

trabaja para ofrecer un servicio sanitario de la mejor calidad en el nuevo hospital de urduliz

creemos en el modelo de gestión en el que osakidetza viene aplicando en todos los hospitales comarcales

san eloy de barakaldo todos esos están exactamente igual que lo que hemos planteado para el hospital de urduliz desde hace un montón de años

tiene la responsabilidad y el deber de organizar los servicios del modo más eficaz y eficiente para garantizar calidad y sostenibilidad

en su actividad principal las sanitarias sin desmerecer el resto un planteamiento por otro lado que no es exclusivo de osakidetza es hoy en día la orientación más generalizada no en

y no me refiero solo a las gestionadas por este gobierno pregunte usted en el ayuntamiento de madrid cómo tiene la limpieza o en el de barcelona o incluso puede preguntar usted a las propias organizaciones sindicales que suscribieron los acuerdos de no externalización del dos mil ocho

limpian sus sedes sindicales con empresas de limpieza externas el empleo no se crea solo en el sector público

pero tenemos que decir que en este caso los alaveses y el conjunto de los enanos vascos porque al final es una infraestructura de mejora no solo de la sanidad en álava sino en el conjunto

prácticamente fueron dos obras que empezaron a la vez y desde luego

le queda todavía mucho y desde luego no se están cumpliendo los compromisos ni los propios plazos previstos en los planes en el plan funcional que ustedes modificaron no sé si eso tuvo que ver en el retraso de la ejecución de las obras en esta infraestructura o el propio plan director

este año se haya presupuestado una cantidad inferior me va a decir que lo que tienen pensado acometer este año

inversión pero es menor a la del año pasado el año pasado fueron doce coma cinco millónes de euros este año siete pero lo que nos ha llamado también la atención es que el año pasado

en esta legislatura un crédito de compromiso de dieciséis millónes y ese crédito de compromiso que ustedes tenían previsto en el resto de infraestructuras no solo se ha

como ya le hicimos porque esto es un tema recurrente señor consejero ya le preguntamos en el mes de julio de si no consideraba la prioritaria

le volvemos a preguntar por lo mismo si sigue considerando no prioritaria

garrido anderea soy plenamente consciente de su interés

parece que exclusivamente en álava pero créame no tiene su señoría más interés que el propio gobierno eusko jaurlaritzarentzat lehentasunezkoa da

garrido anderea desde el comienzo del anterior legislatura

y mejorando el sistema sanitario en álava pese que algunos les pese y vamos a seguir haciéndolo a lo largo de esta legislatura inversiones en atención primaria

para dotar a álava de la sanidad pública de presente y futuro que los alaveses y alavesas merecen en álava como usted conoce bien la pasada legislatura se invirtieron veintiséis coma uno millónes de euros la mayoría

y próximamente en abril iniciaremos las obras de derribo de una parte de txagorritxu

asistenciales una inversión que se acercará a los cincuenta y cuatro millónes de euros el gobierno vasco y el departamento de salud tienen muy presente a los alaveses y alavesas y trabajan para ofrecerles una sanidad pública de la mejor calidad

bueno señor consejero lo que pasa que al ritmo que van las obras desde luego no sé si usted va a tener la suerte de inaugurar las obras del hospital universitario de álava

tuvo la suerte de inaugurar el edificio de consultas externas pero claro también hay que decir que el edificio de consultas externas

que planteamos incrementar la inversión inicialmente prevista en el pacto con el partido socialista

nueve millónes de euros que posibilitaron acelerar esa inversión haremos lo propio estos presupuestos creo que esta vez usted mirará con más atención la enmienda que le presentemos en relación a incrementar la inversión en el hospital

y que como consideramos que esta es una obra prioritaria como lo era el hospital de urduliz que está muy bien como es biocruces como es el hospital de eibar en donde por cierto se respetan los créditos de compromisos previstos

mayores dineros para poder acelerar esa inversión hombre lo que sí llama la atención es con los siete coma cinco millónes presupuestarios y los treinta meses en los que usted

cuando el montante total de este presupuesto es cincuenta y cuatro y con la demolición cincuenta y cinco millónes de euros no sé cómo lo va a hacer desde luego

siguen ralentizando y desde luego no ejecutando los ritmos de las obras en la infraestructura esencial estratégica no solo para la sanidad en álava

el país vasco como es el hospital universitario de álava señor consejero cómo en treinta meses va a ejecutar cincuenta y cinco millónes si

esas cuestiones ustedes con ese gran presupuesto que hay en sanidad de lo cual nos alegramos
podrá sacar una partida para arreglar el escáner estropeado darpón jauna zurea da hitza

verá que son muchas las mejoras acometidas en los últimos años y a la vista están los alaveses y alavesas así lo aprecian mire en la sede de txagorritxu son nuevos el hospital de día médico

la rehabilitación cardíaca la rehabilitación de pacientes hospitalizados el banco de sangre y se han adecuado el servicio de oncología y urgencias

y apertura de los nuevos laboratorios y de ese edificio que se dice que construyeron con el apoyo de ustedes de consultas externas pero que no llegó a abrirse

en la sede de santiago se han puesto en marcha el centro oftalmológico el hospital de día quirúrgico la rehabilitación los servicios de neurología y neurofisiología la nueva unidad de sueño que tiene usted hoy en el periódico

y actualmente estamos finalizando las obras de la piscina de rehabilitación que acabarán antes de la semana santa y como le he dicho se inician ya las obras de construcción del nuevo edificio de servicios generales del hua después de dar una alternativa

y su alcalde señora garrido a quien desde aquí agradezco su disposición colaboración y compromiso con los equipamientos sanitarios de la ciudad

para albergar las nuevas urgencias generales y pediátricas la unidad de cuidados intensivos

y el bloque quirúrgico con diecinueve nuevos quirófanos

es una realidad palpable en álava más que las consultas externas urte hauetan

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on guztioi en primer lugar quiero agradecerle señora ubera las consideraciones positivas que ha realizado en cuanto a la decisión

de realizar desde la inspección de trabajo una campaña específica para que en dos años seamos capaces de revisar el grueso de la contratación a tiempo parcial en euskadi atajar el fraude laboral es un compromiso no solo del gobierno vasco sino de todos los agentes sociales

y patronales y hacerlo ejemplarmente a través de los mecanismos que disponemos es una labor que debemos hacer frente en beneficio del conjunto de la sociedad como decía en respuesta a otra compañera parlamentaria

está lesionando los intereses generales perdemos todos y todas

y el conjunto de la ciudadanía porque la administración no podrá devolverle como servicios públicos lo que deja de recaudar vía impuestos con todo el respeto señora ubera permítame que le diga que su iniciativa mezcla dos materias que no puede identificarse como similares usted suma

otra que debe dirigirse a lo que denomina fraude en la contratación de empleo público me gustaría detenerme en este punto para aclarar algunas cuestiones al respecto

en la contratación en el sector público y también admito que la interinidad se ha prolongado más de lo deseable pero tengo que indicarle que esta situación no gusta al gobierno vasco que no obedece

tenga la seguridad señora ubera que no es una estrategia del gobierno vasco para entrecomillo ahorrar dinero

de las y los trabajadores que acceden a un empleo público no le quepa la menor duda de que apostamos por el empleo estable y de calidad

las tasas de reposición en el empleo público han limitado las posibilidades de realizar ofertas de empleo público que son las herramientas más eficaces para operar una clara disminución de la temporalidad y la interinidad estamos de acuerdo en que es necesaria la adopción de acuerdos en la mesa general de función pública y en las sectoriales

convocar cuanto antes más ofertas de empleo público que complemente las que como usted sabe ya están en marcha

quienes puedan contar con esa eficaz herramienta de creación de empleo y de superar precariedades actuales cuando ustedes reprochan al gobierno vasco esta situación

de las ofertas de empleo público pueden realizarse sin tener en cuenta los límites que se establecen por parte del gobierno de españa a través de los presupuestos generales

no es precisamente pasiva hoy se está solicitando por parte de las organizaciones sindicales además de la eliminación de la tasa de reposición una oferta de empleo público excepcional

ocupados en el sector público por trabajadores temporales interinos o vacantes

es esta una realidad que no afecta exclusivamente a nuestra comunidad y una realidad cuya superación llegará a través de la convocatoria de ofertas de empleo público se refiere usted en la justificación a esta interpelación en la situación general tanto en osakidetza como en educación

la situación de temporalidad en estos dos colectivos como usted bien sabe se debe a las especiales características de los empleos en los dos casos hay evidencias claras de que se están adoptando medidas para superarla es un compromiso del conjunto de gobierno en el caso del departamento de educación sabe usted perfectamente

a una oferta de empleo público para setecientos cuarenta plazas para los niveles de educación primaria e infantil osakidetza está finalizando el proceso de la ope de dos mil quince y este mismo año se convocará

pero para que sea consciente del empeño en el que estamos inmersos los responsables del gobierno vasco permítame que le traslade una consideración personal en la reunión de la conferencia

en madrid pedí acumular a la oferta de empleo público de dos mil dieciséis dotada con ciento seis plazas la del dos mil diecisiete todavía por determinar las plazas que se van a ofertar

también se refiere usted a las reclamaciones y demandas que se están tramitando solicitando indemnizaciones similares para los trabajadores y trabajadoras que son despedidas después de haber tenido un contrato temporal que para los que tenían un contrato indefinido estas demandas efectivamente están soportadas en una sentencia del tribunal europeo de justicia y aquí señora ubera vuelve usted a mezclar asuntos de diferente condición

con el hecho de que ese contrato fuera temporal en base a las necesidades de servicio que

sinceramente estoy segura que para solucionar el problema que usted plantea tenemos medios y herramientas suficientes en el ámbito de nuestra administración coincidimos en que tenemos un problema el de la temporalidad e interinidad en el empleo público por parte del gobierno vasco vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para ofrecer una solución a través de las ofertas de empleo público y contamos con un

que es la mesa general de la administración y las sectoriales para dar cauce a esa y otras posibles soluciones para finalizar tengo que decirle señoría que la situación que usted y yo hemos

nuestro objetivo es abordar el problema en el conjunto del sistema pero vamos a prestar especial atención a las situaciones que nos parecen más vulnerables estamos hablando de personas que por necesidad son obligadas a firmar un contrato con determinadas condiciones y a trabajar con otras de colectivos que tienen respaldo sindical nulo o insuficiente

actuaciones en los sectores más propensos a cometer irregularidades en definitiva queremos determinar de la manera más precisa posible

y usted es perfectamente consciente de que ese hipotético fraude a la jornada pactada en contrato

que cuenta con sistemas de control tanto propios como los que llevan a cabo los sindicatos haciendo inviables prácticas fraudulentas esto no quiere decir en absoluto que no vayamos a actuar en todos los casos en que se refiera la intervención de la inspección de trabajo eskerrik asko

andrea ubera andrea zurea da hitza señora san josé usted me ha hablado de hacerlo

una cuestión de políticas de actitud mucho más profundas porque estamos hablando de una cuestión

he querido tratar el tema que me plantea desde la racionalidad señora ubera

y no huyendo del problema de la temporalidad que tenemos asegurando que queremos avanzar y lo haremos desde el gobierno vasco con las ofertas públicas de empleo que se determinen

de negociación lo que me gustaría es que quedara claro el sentido de nuestra campaña y que entendiese sus objetivos y alcance

se marcan prioridades en las acciones a emprender las cuales irán dirigidas para obtener mejores resultados allí donde se detectan más problemas

estará de acuerdo conmigo en que hay más problemas para atajar en el ámbito empresarial privado problemas que son de diferente naturaleza insisto señora ubera

más vulnerables donde los trabajadores y trabajadoras están más desprotegidos donde no cuentan con representantes que puedan defender sus derechos y donde apenas

le invito señora ubera a que pregunte a los trabajadores y trabajadoras vascas sobre dónde consideran que hay mayor inestabilidad y dónde pueden concentrarse los problemas que hoy planteamos

dónde creen que es prioritaria la actuación de la administración estoy segura que la mayoría comparte la preocupación e iniciativa que hemos adoptado en el departamento de trabajo y justicia la inspección de trabajo no puede ni debe cerrar los ojos en ningún sector y nosotros no dejaremos que lo haga

salvo los casos de nombramientos de funcionarios interinos sobre los cuales sabe que no tienen competencia de todas formas quiero insistirle en la voluntad de este gobierno para dar

en el personal público que trabaja en la administración de la comunidad autónoma del país vasco somos conscientes de la necesidad de reducir la temporalidad de consolidar los puestos de personal

también estamos comprometidos con acabar con las desigualdades de género que se detectan

adecuando los puestos de trabajo a las nuevas tecnologías y demandas de la administración electrónica

grandes oportunidades para hacer leyes adecuadas a las necesidades del momento

el objetivo último de estas iniciativas legislativas es que los trabajadores y trabajadoras que presten servicios públicos lo hagan en las mejores condiciones posibles

ante los ciudadanos aumente hagamos posible esto entre todos y mientras tanto no lo dude actuaremos desde el departamento de trabajo y justicia ante las infracciones denunciadas
porque actuamos con arreglo a lo que dicta la ley eskerrik asko eskerrik asko san josé